que se impide que recibamos lo que justamente nos corresponde que no es más que acceder al sistema de salud y tener garantizado los tratamientos o medicamentos que necesitemos tomar una buena salud o para tener bajo control enfermedades crónicas lo recibamos aunque no tengamos recursos económicos suficientes beste aldetik jaurlaritzak

y no se trata de gastar por gastar el dinero que se prevé en el presupuesto se trata de que si tenemos una población que se puede beneficiar de este tipo de ayudas por pequeñas que sean se trata de intentar que nadie se nos quede en el camino y no solo eso si además podemos ofrecer ese pequeño beneficio a personas que hoy en día no optan al mismo mejor que mejor

en la que nos encontramos posibilita que ese denominado repago farmacéutico

afecte a personas que cada día tienen menos poder adquisitivo a personas pensionistas por poner un ejemplo que ven diariamente cómo su pensión se reduce cada vez más

porque está comprobado que un porcentaje más que considerable de estas personas

y por otra parte las medidas que desde el departamento de salud se pusieron en marcha en el año dos mil trece no

durante la legislatura pasada fueron varias las iniciativas que se debatieron en esta cámara con respecto a este tema

socialista sin demasiado éxito tenemos que decir por eso creemos que ha llegado el momento de retomar el asunto darle una vuelta de tuerca a las medidas que hoy en día tenemos en marcha de revisar la situación siempre con el fin de ir un paso más allá y de beneficiar a las personas que más lo necesitan legislatura nueva

nuevos acuerdos nuestra propuesta en el día de hoy y por ende el acuerdo que hemos firmado con los dos

y con elkarrekin podemos gira en torno a cuatro ideas principales no lo voy a leer literalmente porque para eso lo tienen ustedes a su disposición pero sí voy a intentar explicar

y que además va en contra de todos los principios que deberían de regir un buen sistema de salud

lo cierto es que nosotras creemos que el pp debería reconsiderarlo urgentemente porque si quieren ahogar económicamente a ciertos colectivos deberían cebarse con los que les sobran los euros no con las personas más desfavorecidas

los mecanismos necesarios a la ciudadanía para que ninguna persona se quede sin tratamiento farmacológico que los

además consideramos que esos mecanismos deberían revisarse como decía anteriormente porque tal y como lo hemos dicho las ayudas no están llegando a todas las personas que podrían beneficiarse se dispone de una partida presupuestaria cada vez más pequeño que ningún año se termina ejecutando al cien por ciento

andrea sailburuok osasun sailburuok compañeros y compañeras parlamentarios

contentos de que haya habido un consenso entre cuatro fuerzas políticas del parlamento y eso indica que hay mimbres para poder lograr procesos de pacto en defensa de la sanidad pública vasca en esta legislatura

ha hecho comentarios básicos como proponente

de dicho decreto no voy a decir mucho más pero

alrededor del copago farmacéutico la primera reflexión es de dónde sale el copago la segunda es sus consecuencias y la tercera algunas dudas que tenemos aunque hemos consensuado la proposición no de ley

estas sociedades que nos han tocado vivir se llaman capitalistas

el nombre lo acuñó marx en mil ochocientos sesenta

libro ética protestante y el espíritu del capitalismo consolidaron dicho nombre estas sociedades tienen como elemento central la acumulación de capital en la economía de mercado y dicha acumulación de capital cuando se distorsiona o tiene tasas bajas de ganancia entran

crisis como la última de finales del dos mil en donde según dice

las crisis son inventos interesantes de los listos del mercado porque

recuperar de forma rápida las tasas de acumulación de capital perdida y toda europa se puso en ello y además se pusieron

con un criterio sobre todo la derecha neoliberal con un criterio que es cargar en los sectores más desfavorecidos los costos de la crisis los costos de la recuperación de las tasas de ganancia fueron las reformas laborales fueron los

donde se contiene entre otros el copago farmacéutico

recaer en las poblaciones más desprotegidas los costos de los problemas que el capital ha tenido en su forma de organizar

el copago en sanidad fue directamente

un disparo a los sectores más frágiles más enfermos más vulnerables de nuestra sociedad

en dicho pago se habló inclusive de topes ocho euros al mes

para repagar parte del juego medicamentoso hasta que nos empezaron a llegar algunas encuestas la primera de ellas que nos llegó en más de mil quinientos pensionistas es la obviedad que

que recibían prescripción farmacéutica de sus médicos del sistema público de salud no retiraban

consideró que las distorsiones sociales de la medida que saltaban a la vista porque se puede ser de derechas pero hay que intentarnos ser torpe

consideró que las dificultades de acceso a los medicamentos eran importantes consideró que podían aumentar las desigualdades sociales que ya estaban en la sociedad vasca y en la sociedad española consideró que

los costos sanitarios puesto que si no tienes la medicación oportuna

e ingresan en los hospitales y en nuestro sistema de urgencias y se consideró que estaba aumentando en estos sectores la movilidad las enfermedades y la mortalidad recuerdo que gente de ochenta años en euskadi

y recuerdo que mayores de sesenta y cinco años en nuestra tierra

siendo la franja de población de ochenta años y más la que más crece hasta aquí estamos de acuerdo

un conjunto de reglamentos para garantizar la adhesión y efectivamente tenemos siete millónes y pico para dar cobertura a los solicitantes y a las solicitantes mediante el reintegro de gastos bien en forma simplificada

sus gastos en farmacia nos parece bien tenemos algunas dudas ya se discutió en la legislatura pasada si podía ser un elemento más o menos burocrático sobre todo sabiendo que los enfermos crónicos a los que estamos

mayoritariamente insisto en que la franja de ochenta años y más nuestros enfermos crónicos

con papeles el consejero de salud ha dicho en varias ocasiones que se iba a simplificar el procedimiento burocrático de acceso

de que todos los colectivos afectados por la medida de acceso a medicamentos para sus tratamientos completos sean los que están sabemos que los pensionistas de rentas bajas de rentas hasta dieciocho mil euros están sabemos que

está tenemos más dudas de algunas personas que no son pensionistas que no cobran la rgi que no son prescriptoras pero que sí tienen la tis la tarjeta individual sanitaria porque cumplen los requisitos para ello tenemos algunas dudas

todas las personas que necesitan la ayuda estén en el proceso de reintegro de gastos para cobrar sus facturas y garantizar las medicaciones anulando los efectos perversos de las políticas de copago como bien ha explicado eva blanco nosotros solamente tenemos que decir que sociedades científicas nuestras sociedades de médicos agentes sociales equipos directivos

la única y la primera que intentó paliar de forma suave sin enfrentarse demasiado a nuestro tribunal constitucional

también sabemos que muchas veces que los reintegros de gastos de nuestras familias de nuestros

a muchas familias y a muchas personas mayores enfermas crónicas

nosotros creemos que el gobierno vasco tiene que hacer un esfuerzo no solamente para mantener

en las desigualdades de salud y en nuestras personas mayores además de plantear activamente

sino que además tendría que hacer un esfuerzo y así lo pensamos un estudio comentar con otros consejeros o consejeras la oportunidad de que la mayoría de las personas que están recibiendo

económica de nuestro gobierno sean las adecuadas y que las que faltan se haga un esfuerzo para captación no quiero acabar nada más que

y la rapidez en intentar neutralizar también los problemas del acceso universal

son medidas bienvenidas pero creemos que la torpeza de la actual ministra de salud montserrat

nuevos tramos para intentar colar el copago farmacéutico pues ha logrado un nivel no solamente el mismo partido popular le ha dicho

no te líes con la manta y efectivamente se cayó inmediatamente pero ha logrado un nivel de oposición no solamente unidos podemos en el congreso de los diputados no solamente el psoe

la mayoría de otras fuerzas políticas están en contra del copago farmacéutico acabamos pues

esta ley y animando al gobierno a que haga un esfuerzo para buscar la cobertura ni la máxima ni la mínima la cobertura adecuada para que la prestación llegue a quien tiene que llegar y evite así obviamente las desigualdades

eh bildu como decía el señor uria tiene un amplio acuerdo y luego creo que tiene dos objetivos el primero es unir fuerzas para pedir la derogación del medicamentazo del dos mil doce que provocó que miles de familias vascas

y el segundo objetivo es mantener las medidas de compensación que garantizan el tratamiento de las rentas bajas hoy el acuerdo como han dicho ya anteriormente será respaldado por cuatro de los cinco grupos parlamentarios de esta cámara

porque inicialmente no resultó llamativa la justificación de quien presentaba la iniciativa en su punto tercero decía

no han tenido que renunciar a su tratamiento en los últimos tres años la alternativa entendemos era no poder pagarlos y desde luego nosotros no podemos compartir

porque en la justificación se dice que esa compensación se logró por la firma de miles de personas

una de las primeras iniciativas socialistas y que fue rápidamente emulada por algún partido político y fue de lo primero que hablamos entonces en aquella legislatura y perdimos es verdad sí perdimos cuando ustedes y nosotros

dentro de nuestras competencias para impedir el efecto del llamado medicamentazo luego

entendió que debíamos de insistir en lo que hoy seguimos reafirmando hasta que conseguimos hacer cambiar de opinión al gobierno vasco acordamos hacer un decreto de compensación ha sido pionero en españa imitado en otras partes gobernadas ahora por gobiernos que se denominan del cambio

puesto que entendemos que las palabras pueden sostenerlo todo pero hacía falta dinero entonces cuando se abrió la posibilidad de acuerdo en junio de dos mil trece

prefirió descolgarse a pesar de ir en lo que hasta entonces habíamos recorrido juntos a algunos desde la oposición no nos ha importado acordar

y lo hicimos con negociación aunque sea insuficiente aunque uno no consiga todo lo que le gustaría pero cada vez que el partido socialista de euskadi se pone a negociar con otros

mil ochocientos diez familias a las que no les cortan la luz y el agua el año pasado

entendemos que todo eso se gana aunque sea mejorable en una mesa de negociación pero no

a que arbitrara a la mayor brevedad y en el uso de su capacidad de autogobierno medidas de compensación para todas aquellas personas cuyos ingresos sean inferiores a dieciocho mil euros anuales y se encuentren en situación objetiva de enfermedad

desde el uno de julio fecha a partir de la cual se verán afectadas por el repago farmacéutico eso se decía textualmente como si no hubiese un decreto de noviembre de ese año

es insuficiente sí es probable que la población que objetivamente podría beneficiarse

es probable que se pueda agilizar el sistema que se puedan explorar las posibilidades de la receta electrónica

sí es probable por eso en nuestra enmienda decíamos que se siga revisando el sistema pero es justo también y debe ser justo reconocer lo que se ha hecho y lo que además se ha hecho bien los socialistas creemos que es una oportunidad para reiterar nuestro compromiso inequívoco para revertir la situación generada en abril del dos mil doce por el partido popular y es bueno recordar lo que pasaba aquí en euskadi en euskadi gobernaba patxi lópez y diseñó un decreto alternativo

la que nos da nuestro estatuto de autonomía y que va en la línea de lo que aquí se nos propone hoy cinco años después pero es aquella fórmula

por el tribunal constitucional y como todos sabemos aún no ha sido resuelto inmediatamente los socialistas ya en la oposición propusimos que mientras se resolvía el fondo mientras está en suspenso la decisión del gobierno vasco socialista

se buscaran otras fórmulas sin riesgo jurídico que es la que tenemos así que este debate es un intento por dejar a alguien en evidencia entendemos no será a nosotros

reiteramos que el derecho a la salud universal gratuita y de calidad

y las competencias propias y el modelo vasco para desarrollar este derecho están en el estatuto de autonomía

y en la de ordenación sanitaria y lo que queremos y hacemos en la medida en que es

es hacer uso de hasta la última de nuestras competencias para hacer valer esos derechos no nos hemos quedado en el rechazo al repago que reiteramos por ser una medida profundamente injusta y contraria a nuestro modelo gratuito público y universal de salud donde nadie que lo necesite debe quedarse

ni sin el trámite que le hayan prescrito los médicos no nos hemos quedado en lo superficial y hemos diseñado un modelo de compensación imperfecto

para los socialistas vascos es además la esencia del autogobierno como nosotros lo entendemos como lo estamos haciendo en otras materias sin quedarnos solo en la mera reivindicación

y en ese asunto de repago defendiendo y haciendo lo mismo cuando gobernábamos

la iniciativa que hoy nos presenta eh bildu la parte más positiva es que nos reiteramos en lo ya debatido y defendido la legislatura pasada que cuatro de los cinco grupos de esta cámara

en la votación de esta iniciativa los socialistas vascos en esto tenemos pocas esperanzas

a esta votación mayoritaria y que volverá a defender lo que el señor rajoy defiende en madrid nada más y muchas gracias eskerrik asko rojo andrea

edonola nahi ere bai el grupo proponente en su justificación señala que como consecuencia

quedaron fuera del sistema de protección de la seguridad social más de cuatrocientos medicamentos que pasan a ser abonados al cien por ciento

la retirada de la financiación pública de esos medicamentos no es una medida ni del copago ni del repago

no financiados por el sistema nacional de salud que es de aplicación en nuestro territorio los motivos de su retirada han sido la falta de eficacia contrastada o la existencia de fármacos con la misma eficacia pero con menor coste ello no supone

ni un detrimento en la calidad de los mismos las

cuentan con fármacos igual o más efectivos el decreto hablar de nuevos copagos porque el copago de algunas medicaciones

lo que el decreto establece son nuevas medidas de copago ante las que tanto nuestro gobierno

el departamento de salud liderado por el partido nacionalista vasco ya en la anterior legislatura estableció una serie de medidas destinadas a garantizar

por toda aquella persona que tuviera dificultades económicas para ello pueden gustarle

pueden pensar que sea haga así o que sería mejor hacerlo de otra forma

constructivas y garantizables son bienvenidas pero no se puede decir que ha fracasado el sistema que no ha conseguido llegar de forma directa a todas las personas beneficiarias tal vez no ha conseguido llegar a todas las potenciales beneficiarias pero eso incluye aquellas personas que pudiendo tal vez haberse beneficiado de las ayudas han decidido

la solicitud no es cuestión de dotación solamente las ayudas destinadas para la adherencia al tratamiento llegan a toda aquella persona

a todas sí deben ser solicitadas por la persona beneficiaria porque es la forma de garantizar que no sea una medida recurrida por el gobierno central a nuestro gobierno también le gustaría

el acceso a todo tipo de tratamiento farmacéutico así lo seguiremos reivindicando sin renuncias pero entre tanto las cosas cambian

en las actuales circunstancias normativas lo que nos aplicamos es en dotar a la ciudadanía vasca de medidas prácticas reales y garantizables

es imprescindible que exista una solicitud expresa y firmada no es ninguna exigencia innecesaria del departamento de salud la receta electrónica extendida en todas las oficinas de farmacia en nuestra comunidad permitiría

no hay problema pero saben lo que ocurriría ocurriría que estaríamos conculcando el real decreto ley dieciséis barra dos mil doce abriendo la vía del recurso

por parte del gobierno central en el tribunal constitucional queremos eso entendería la ciudadanía que pusiéramos en riesgo

de los colectivos más vulnerables por gestionarla incorrectamente creo que no y esa sí sería no lo olvidemos responsabilidad

que las medidas propuestas a la ciudadanía por nuestro gobierno deben de contar con suficiente garantía y rigor jurídico

copago farmacéutico pero que hay que indicar que copago farmacéutico ha existido siempre es decir el copago farmacéutico no aparece con el real

dos mil doce de medidas destinadas a garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud el copago farmacéutico existe desde hace más de cincuenta años

mil novecientos sesenta y nueve lo único que intentó y creo que además a tenor de los resultados a los que luego me referiré el citado real decreto es garantizar con una serie de medidas en distintos ámbitos la sostenibilidad y la viabilidad del sistema nacional de salud como decía nuestro sistema nacional de salud es un modelo de referencia un modelo de referencia

más valorado por los ciudadanos y además ha sido gracias al triunfo y es un triunfo de todos de los diferentes agentes que interactúan en el ámbito de la salud

y profesionales y agentes como digo de distintos ámbitos y nuestro sistema afortunadamente y lo va a seguir haciendo

pública gratuita universal y de calidad inolako zalantzarik gabe esan dezakegu gure sistema sanitarioa

el sistema nacional de salud los sistemas nacionales de salud tienen que hacer frente a los diversos retos uno de ellos el más importante es hacer frente al reto demográfico

somos más longevos eso está muy bien pero eso conlleva abordar necesidades en el ámbito sociosanitario y específicamente en el ámbito

hay tres millónes de personas mayores de ochenta años nueve millónes de personas mayores de sesenta y cinco años que en el año dos mil cincuenta serán dieciséis millónes de personas es decir la tercera parte de la población

eso es gracias a todos los avances de la sociedad

hay que ocuparse de las personas que viven más tiempo con más necesidades en el ámbito de la salud con más necesidades en el ámbito de la cronicidad en el ámbito de la dependencia incluso con el abordaje de pluripatologías porque ya además las personas y viendo además que cada vez hay más personas que viven más de ochenta años incluso ya de cien años pues como ustedes comprenderán hay que abordar ya no solo una sola enfermedad sino distintas

y el reto de los gobiernos es precisamente abordar

con seriedad con rigor y eso es lo que hizo el partido popular impulsando el real decreto

de salud por cierto las comunidades autónomas y esto ya lo he repetido en más de un debate

solicitaban medidas a los sucesivos gobiernos

precisamente para dar estabilidad a la financiación

sanidad por lo tanto tenemos que decir que este real decreto avanza claramente en la universilización de la asistencia sanitaria

con el fin de garantizar una equidad en el acceso a las prestaciones se diferencia por lo tanto lo que es la cartera básica de una cartera complementaria

de compras centralizadas que ha traído muchos ahorros

del sistema nacional de salud garantizando la cobertura de los desplazamientos en definitiva han sido medidas que han ido destinadas a garantizar la consolidación del estado de bienestar y de la sanidad como uno de los pilares del estado de bienestar

lo que tratan de hacer todas las medidas que se contemplan en este real decreto y específicamente también las

lo que se hace es distribuir los nuevos criterios del copago para que el sistema sea más justo más equitativo y hacerlo sostenible lo que se hace

en el copago farmacéutico en relación no solo a la edad sino a la renta y también a la situación del grado de la cronicidad de la enfermedad

si no es más justo que los pensionistas que antes todos estaban exentos por igual de pagar las medicinas y tenían las recetas de color rojo díganme señorías si no es más justo que los pensionistas y teniendo en cuenta

y los nuevos criterios la situación de las personas más vulnerables y de los pensionistas más vulnerables se establezca un pequeño copago

una diferenciación entre las rentas entre los distintos pensionistas porque a nadie se le escapa

en este país los pensionistas díganme si no es más justo que las personas

a percibir un subsidio ahora no abonen nada cuando antes abonaban el cuarenta por ciento es que antes las personas que se quedaban sin subsidio de desempleo

en este real decreto no pagan nada por lo tanto señorías creo que el sistema ha arbitrado una serie de medidas que lo han convertido sin duda en un sistema más justo

las personas por discapacidad en los supuestos determinados en la normativa específica

personas preceptoras de pensiones no contributivas no todos los pensionistas pagan pagan en función de la renta y están exentos específicamente los

y miren también el sistema aparte de arbitrar medidas o nuevos criterios en la distribución del copago

porque copago vuelvo a insistir farmacéutico ya existía lo que también ha sido una de las virtudes

de estas medidas ha sido corregir las ineficiencias y los abusos

es que cuando se promulga este real decreto la deuda

es que la situación en el dos mil doce era que anualmente

en los hogares españoles es que todos los años

al año iban al punto sigre punto de recogida en las farmacias y el coste

yo creo que aquí cada uno además podemos hacer un ejercicio también de autocrítica y repasar

almacenábamos muchos de ellos ya caducados y desde luego que no podían ser utilizados en desuso nuestras casas por lo tanto creo que los beneficios de este sistema han sido importantes aparte del ahorro que ha posibilitado

las medidas puestas en marcha y gracias al ahorro que se ha conseguido se ha conseguido revertir esas cantidades en innovaciones por ejemplo terapéuticas con nuevos tratamientos para

hay que decir que afortunadamente en españa no existe copago hospitalario pero miren es que copago hospitalario en muchos otros países muy cercanos a nosotros

por una prueba de laboratorio por una radiografía por un transporte sanitario

en españa por lo tanto podemos afirmar con orgullo que la sanidad es gratuita universal y de calidad

tengo que decir y voy finalizando señora presidenta que obviamente no podemos suscribir la enmienda de transacción firmada por todos

de este real decreto que nosotros y no nosotros sino que ahí están los datos en los que me

positivos se ha garantizado la sostenibilidad de nuestro sistema nacional de salud ha posibilitado ahorros

eskerrik asko berriro señora garrido le ha dedicado usted treinta segundos al acuerdo y el resto de su intervención

justificar y es que por mucho que usted lo vista siempre utiliza los mismos argumentos fíjese si utiliza siempre los mismos argumentos

siempre tres años utilizando los mismos argumentos que parece ser que aquí se acumulaban toneladas y toneladas de medicamentos y la sostenibilidad el problema señora garrido es que el partido popular para garantizar esa sostenibilidad que ustedes venden utilizan como pilares a las personas

más vulnerables y utilizan como pilares al sistema de cohesión social ese es el problema ahí es donde ustedes justifican la sostenibilidad como digo tres años sin innovar veremos en el siguiente debate

recuento más o menos de las iniciativas que se han debatido en este parlamento la legislatura pasada ya lo he dicho yo también es cierto se presentaron algunas

otras conjuntamente y luego usted dice que aquí cada uno se fue por su lado no hemos intentado llegar a puntos de acuerdo y le voy a recordar

mire señora rojo ocho de febrero de dos mil dieciséis

último acuerdo firmado eh bildu grupo socialista febrero de dos mil dieciséis a las dos les quiero recordar a las dos no a toda la cámara que han sido muchas

grupos de pensionistas tanto a hablar a nivel particular como en las comisiones

y en las comisiones todos que sí que sí y luego cuando salían por la puerta si le he visto no me acuerdo tanto la señora rojo como la señora

mención a la justificación de nuestra proposición no de ley se han detenido también un buen rato las dos portavoces a explicar o a intentar explicar nuestra justificación de la proposición no de ley la señora sagardui también ha hecho una corrección la cual le agradezco yo siempre digo que aquí

y que poco al acuerdo qué poco al acuerdo

porque ahí es donde está la novedad decía la señora rojo que no que es que estamos manteniendo y

la novedad está en el punto cuatro en el punto cuatro está la novedad que por cierto entiendo también que la señora garrido vaya a votar en contra porque claro si han ustedes intentado

cómo van a admitir que los perceptores y perceptoras de rgi tengan más derechos les voy a recordar el decreto

que hay que modificar hirugarren puntua pertsona onuradunak

laguntzetara sarbidea emate aldera ahí es donde está la diferencia señores y señoras con este acuerdo intentaremos dar cobertura a más personas nos parece un buen acuerdo no quiero terminar con este mal tono quiero terminar agradeciendo de nuevo la disposición de todos los grupos excepto el partido popular

transaccional creemos que es un acuerdo bueno creemos que es un acuerdo valiente y creemos que es un acuerdo además absolutamente necesario eskerrik asko

andrea está bien el acuerdo

para garantizar la adhesión a los medicamentos y a su toma por parte de los sectores afectados por el decretazo

que se haga más atención a donde es más necesario los promedios en los datos siempre esconden desigualdades

nosotros sabemos dónde están las personas más mayores de euskadi

pero basauri y portugalete son veinticinco por ciento bilbao veintitrés por ciento

sabemos dónde están las personas mayores sabemos dónde están los enfermos y las enfermas crónicas porque tenemos insisto sistemas de información

con los datos que tenemos desagreguemos los datos y trabajemos y captemos a aquellas personas que están pobres frágiles enfermas

proponemos estudiar los colectivos más vulnerables que no están actualmente en la cobertura sabemos

el que solicita lo tiene los procesos de accesibilidad en la administración pública vasca tienen que ver con la burocracia y con las culturas elementos que hay que considerar además de los problemas económicos en la accesibilidad a servicios públicos

en los manejos de los papeles y en los manejos informáticos hay que considerarlos como el analfabetismo de un sector de nuestras poblaciones mayores en el manejo de los software que tiene

por lo tanto no hagamos complacencias de asuntos que están bien vamos a hacerlos mejor y vamos a hacerlos mejor por acuerdo de los grupos

del decreto la mayoría de las comunidades autónomas del partido popular no pusieron en marcha otros cuatro copagos

el copago a transporte no urgente sanitario el copago alimentación y el copago a prótesis era tan absurda la medida

para pagar los recortes era tan absurda que los mismos gobiernos de las comunidades autónomas nunca menos melilla y ceuta que yo tenga información

es dudoso y existen algunos datos y algunas investigaciones estamos esperando conocer los datos digo para decir tan alegremente que el copago ha colaborado en el ahorro en las políticas sociales para pagar los recortes es más que dudoso así lo dice la asociación de economistas para la salud

en los procesos de copago farmacéutico inclusive algunos datos ya señalan que por el disparo de gastos sanitarios de costos sanitarios precisamente por la no adhesión a medicamentos esos supuestos ahorros no se conviertan en más gastos tenemos algunos documentos todavía no podemos

toda la información que hay de que estos sistemas de copagos en general en europa y específicamente en el estado español sirvan para ahorrar aún más algunos cargan nuestras instituciones públicas y algunos disparan los costos y respecto a medicamentos yo no sé porque este gobierno de madrid

acepta cinco mil medicamentos no sé por qué necesitamos quince mil medicamentos nuestra gente necesita los medicamentos

probablemente hay bastante tarea que hacer en lo que se llama todavía el uso racional del medicamento que sin duda esperemos que nuestros centros de salud y nuestros servicios hospitalarios en las osi hagan lo que se llama la cancelación terapéutica o coordinación

gracias otra vez presidenta muy brevemente porque creo que

y señora blanco hoy no es el día para que usted y yo discutamos he puesto en valor el acuerdo he dicho que era importantísimo que cuatro de los cinco grupos parlamentarios lo hayamos firmado

y no es justo que usted diga que los grupos parlamentarios escuchamos a los colectivos y sí sí sí y no no no porque no es real porque quien hizo el decreto alternativo fue el señor patxi lópez cuando era lehendakari por tanto sí sí sí se les dijo y sí sí sí por tanto creo que la historia por sus hechos se les conocerán y nosotros cumplimos con los compromisos que adquirimos con los colectivos que como ustedes nos reunimos en los despachos

comisiones parlamentarias por lo tanto creo que es justo reconocer

y cuando he dicho que ustedes decidieron descolgarse he dicho que en el año dos mil trece hubo una posibilidad de acuerdo en junio de dos mil trece en relación con este tema

siempre en todos los acuerdos en aquel momento ustedes sabrán por qué decidieron descolgarse eso es lo que he dicho pero aun con todo eso

aun con la historia hoy celebro el acuerdo eso es lo que he venido a decir en mi primera intervención porque entendía que no es hoy el día para que eh bildu y el partido socialista

a la hora de plantear el tema porque por eso le he explicado que el punto tres de su iniciativa no lo podíamos compartir porque tal y como he dicho yo misma y la señora sagardui

se han mejorado cosas seguramente se pueden seguir mejorando y espero que ahí nos sigamos encontrando ustedes y nosotros y señora garrido usted decía hablaba de cuál era la medida más justa o más injusta y

desconocidos en este tema y en otros usted sabe que el decreto que aprueba el gobierno de españa con el señor rajoy como presidente y con la señora mato en aquel momento como ministra lo que hacía era dejar a las familias vulnerables una vez les hacía más vulnerables que como estaban inicialmente

igual que yo el partido popular justificaba este decreto diciendo que era caro e insostenible y que había que buscar la fórmula para poder ayudar a la gente y usted sabe que esto no es cierto

y no como una medida económica porque ustedes cuando justificaban que el sistema sanitario de españa

cualquier estudio que usted coja que están colgados en las páginas webs de las comunidades autónomas y del propio ministerio dice que es de los más baratos del entorno

insistiendo en el tema a sabiendas de que todos los grupos políticos en las comunidades autónomas y en el propio congreso de los diputados hoy estamos en contra agarrándose de la ideología me parece respetable pero defiéndanlo como es no quieran justificar una medida que toman

que es lo que ustedes han hecho haciéndole mucho más vulnerable han cogido la crisis económica como la excusa para intentar

en la que entienden que si acaban pagando los de siempre pues se acabarán beneficiando también los de siempre

pero que quienes estuvieron defendiendo este tema en la legislatura pasada y la anterior lo hacían y por qué digo esto porque efectivamente algo bueno aunque creo que más de una cosa hay hoy en el congreso de los diputados que ustedes acabarán teniendo que quitar esta medida que pusieron en su día en marcha igual que les está pasando

ahora están en minoría han intentado utilizar la crisis económica para llevar su ideología a las casas de la gente

y lo que no entienden es que todas las comunidades autónomas están en contra incluso aquellas que lideraba el partido popular porque cuando tú no tienes que gestionar y dar la cara en la calle con sus ciudadanos

en sus autonomías y estaría bien que escucharan que se vinieran al acuerdo

para pedir junto con todos los grupos parlamentarios de esta cámara que la derogación del medicamentazo sería una de las próximas medidas que debiera de poner en marcha el señor rajoy

defiéndanlo pero no quieran tapar esto de medida económica porque usted sabe que si se compara el sistema sanitario español con el resto del entorno

de salud mucho más tiempo que yo que la economía en este caso no es la excusa muchas gracias

bueno por empezar por el señor uria decirle que según distintas encuestas y distintos estudios y lo propio que afirma la ocde

habitual de la falta de adherencia a los tratamientos

hacía referencia españa es uno de los tres países

se alegan problemas económicos para acceder a tratamientos farmacológicos junto a suecia o reino unido por lo tanto no se estarán haciendo las cosas

le ha quedado claro después de mi intervención que desde luego no estamos ante un repago no se ha instaurado ningún copago sino que se han establecido unos nuevos

más sostenible y más equitativo o acaso señorías me van a decir que no es más justo que los desempleados sin prestación

por ciento de las medicinas con un gobierno del partido popular hayan pasado a pagar cero euros o acaso

su pago a los medicamentos de acuerdo a la renta

congelar las pensiones a los pensionistas porque el único gobierno de este país en la historia de este país que ha tenido el honor de congelar las pensiones

esos sectores tan vulnerables a los que usted hacía referencia y que nosotros desde luego compartimos son los que ustedes únicamente como único partido las pensiones por primera vez en la historia de nuestro país señorías la situación heredada por el partido popular

millónes de euros de deuda sanitaria también esa fue una de las herencias socialistas

el partido popular cuando se hizo el traspaso de poderes por no recordar también las ineficiencias que había en la utilización de los medicamentos las tres mil setecientos toneladas que iban al sigre también el turismo sanitario los

al año y vuelvo a recalcar señorías todos ustedes saben

existe copago farmacéutico en este país desde el año mil novecientos sesenta y nueve y afortunadamente tenemos el orgullo

de decir que nuestro país no existe copago por la asistencia sanitaria como sí existe en otros países vecinos miren en países como alemania austria bélgica finlandia noruega suecia irlanda grecia portugal y francia

atención primaria por la atención hospitalaria por la atención médica

les he dicho en francia uno euro por ir al médico por hacerse una prueba de laboratorio por una radiografía

en bélgica de uno a seis coma cinco euros por ir al médico y la tarifa de hospitalización en austria son diez euros

de las medidas impulsadas por el partido popular para precisamente garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud ha posibilitado buenos resultados ahorros seis mil seiscientos veintiuno millónes de euros y estos son datos señorías y es que ustedes

un sistema unas medidas pero no me han dicho ningún resultado

entre julio de dos mil doce y diciembre de dos mil dieciséis esos ahorros son los que han posibilitado innovaciones terapéuticas en nuevos tratamientos para tratar el cáncer

la disminución de la deuda de la industria farmacéutica señor uria yo pensaba que algo de esto sabía

la reducción de los días de demora en el pago de quinientos veinticinco días en dos mil once a noventa y cinco días actualmente la disminución

en oficinas de farmacia el aumento de consumo de los medicamentos genéricos

y que han posibilitado ahorros y esos ahorros han permitido

hayan tenido mejoras en sus tratamientos sanitarios

españa sigue liderando y nuestro sistema nacional de salud sigue liderando el ranking

somos modelo somos primeros en el ámbito de la donación y de los trasplantes y yo creo que eso tiene que ser un orgullo y por finalizar señora presidenta

los tribunales avalaron las medidas en relación a los nuevos criterios del copago farmacéutico señaladas en el real decreto yo

interponiendo un recurso pero también sé que el señor bengoa cuando se le preguntaba sobre estas cuestiones y fue consejero con el partido socialista decía que era

y también nos decía el señor bengoa en una entrevista que la decisión tenía que ser nacional y que los pensionistas con rentas altas deben pagar los medicamentos estoy hablando de asegurar la progresividad igual que se hace en las políticas fiscales eso decía

garrido andrea iba a interponer el recurso y por finalizar señora presidenta

el reto de la demografía hubiera asistido

que en ella estamos representando venimos mostrando la preocupación ante la situación que padecemos por el uso del amianto entre los años sesenta y noventa principalmente y que nos ha dejado un problema importantísimo

las personas afectadas porque trabajaron con amianto porque inhalaron amianto porque vivían en entornos con amianto en el aire porque eran familiares o porque simplemente lavaban la ropa de estos trabajadores por otro lado el amianto
isiltasuna mesedez que hay en muchas construcciones en muchos espacios
suelos industriales con determinadas actividades en tuberías en conducciones de agua que tienen elementos con amianto y esto es un

es tóxico cuando se manipula cuando se corta cuando se cepilla pero el amianto no se destruye es imposible o muy dificultoso

tenemos una carga de toxicidad que si no se toca que si no se altera no produce toxicidad el problema es que no sabemos

investigar en esta cámara hemos trabajado en una ponencia enfocada principalmente en cómo compensar a las personas afectadas a los trabajadores que han estado expuestos

la creación de un fondo de compensación fondo que sirva para resarcir a los afectados en parte el daño sufrido por la exposición al amianto y por el daño de las secuelas que les ha dejado a muchos de ellos esta iniciativa está encauzada

su debate oportuno y que concluya con una propuesta positiva para resarcir esos efectos que ha provocado a los afectados expuestos al amianto

desde la asociación de afectados por amianto ya nos han expuesto en diferentes ocasiones otros aspectos importantes que les preocupan

que no se cumple en la mayoría de nuestros municipios solo cuatro ayuntamientos

hay otros que están haciéndolo están en trámite por ejemplo llodio o san sebastián

se reclamó en esta cámara por unanimidad en mayo de dos mil dos en dos mil dos esta cámara ya se pronunció unánimemente

un mapa de amianto y fíjese cómo estamos cuatro ayuntamientos y otros en elaboración

es muy importante contar con la información más completa como les decía es muy importante herramienta de los mapas porque sabemos podemos apreciar dónde está el amianto localizado y podemos actuar de manera preventiva no como está pasando

altza que han empezado a hacer uno nuevo y de repente se han encontrado que en la base de ese edificio pues ha habido en su día una industria que dejó restos de amianto y ahora

tienen un problema importante si se hubiese sabido previamente que ahí había esa cuestión

por lo tanto es muy importante tener los mapas por qué es tan importante como les decía básicamente porque el amianto está

que era legal en su momento y que después en el año dos mil uno en españa dejó ya

en casas en pabellones en fábricas en tuberías en uralitas en aislantes

está ahí que no pierde fuerza y que cuando se mueve

por lo tanto está latente y ese es un problema que si no lo quitamos seguirá ahí permanentemente la unión europea en un informe del año dos mil trece decía que el objetivo era que en el dos mil treinta y dos

por lo tanto como les decía nosotros queremos impulsar o colaborar con los ayuntamientos que el gobierno colabore con los ayuntamientos

la información en este caso puede salvar a muchas personas a muchas personas puede salvar la vida a otras les puede salvar evitarles los efectos de toxicidad y de mala salud que provoca el amianto nosotros lo que en

en la legislatura anterior que el gobierno vasco elabore un plan de atención a los afectados del amianto en su día

esta legislatura la hemos vuelto a presentar y hemos visto una posibilidad que el gobierno abre un espacio para poder hacer políticas en favor de

rebajar el volumen o por lo menos tomar medidas para hacer en este caso los mapas del amianto que osalan o que el gobierno colabore porque como les decía hay ayuntamientos que en este momento están elaborando los mapas y la verdad es que no tienen la colaboración que les gustaría

ha tomado el acuerdo de hacer una comisión de los miembros de la corporación para hacer el seguimiento

de este espacio del polideportivo de altza y décimos yo

que sean los que realmente avalen los trabajos que están haciendo que tiene que haber unos equipos técnicos municipales o una formación a los técnicos municipales

los protocolos que se van a llevar a cabo y trasladar esas medidas que se están desarrollando para dar tranquilidad a la corporación

por un lado la elaboración de los mapas de los municipios y por otro la formación y la información el ayuntamiento de san sebastián acordaba entre otros aspectos decía

yo creo que hay muchos ayuntamientos que no están en condiciones de hacer esto

que debe ser osalan quien haga estas campañas de sensibilización es lo que nos dice el sentido común

importante en los ayuntamientos a la hora de afrontar el desarrollo de esta

que si están sin hacer es por la dificultad que entrañan y porque son herramientas que cuestan

para afrontarlas por lo tanto nosotros hemos llegado a un acuerdo con las enmiendas que se presentaron del grupo que apoya al gobierno principalmente

instamos al gobierno por un lado a que se hagan cursos de formación que se intensifiquen los cursos de formación para

los técnicos e intensificar las campañas de información y prevención sobre la exposición de los trabajadores al amianto esta

y por otra parte decíamos el asesoramiento de osalan a los municipios a la hora de desarrollar los trabajos de los mapas creemos que es un acuerdo de mínimos en el inicio de esa colaboración intensa del gobierno con los ayuntamientos y con la sociedad vasca para establecer aquellas herramientas que favorezcan que

que tanto la asociación de afectados nos ha trasladado como debe ser el objetivo de una administración responsable y esa colaboración

por otra parte obligados por ley y nosotros confiamos

inicio de esta colaboración de osalan con los ayuntamientos sigamos avanzando progresivamente

egun on eskerrik asko en primer lugar decir que a nosotros nos parece que hoy también vamos a perder una

muy buena oportunidad para establecer o para marcarle al gobierno las políticas relacionadas con una cuestión que es muy importante y muy grave que es

del amianto creo que vamos a perder una gran oportunidad

a la totalidad porque nos parecía que la propuesta que presentaba el partido popular era

y poco concreta digo poco concreta porque hablaba exclusivamente de un plan dirigido

el discurso del partido popular porque en su propuesta inicial

a esta cuestión que es la relacionada con las víctimas del amianto y a nosotros esto nos parecía muy importante pero nos parecía que hoy el debate tenía que ser sobre la política relacionada con el amianto de manera integral no solo sobre la cuestión de las víctimas frente a una iniciativa que nos parecía insuficiente e inconcreta nos encontramos

enmienda a la totalidad del partido nacionalista vasco y del partido socialista que realmente lo que hacía era tirar balones fuera volver sobre una cuestión

más o menos superada y desaprovechaba la oportunidad de plantear cuales consideran en este caso los grupos nacionalista y socialista

las políticas guías del gobierno en relación al tema del amianto y lo que hacían ustedes era presentar una enmienda donde simplemente

a que realizase el fondo de compensación para las víctimas del amianto nosotros pensamos que esto ya lo hemos hecho es que además lo hemos hecho yo creo que muy bien hemos estado la semana pasada cuatro grupos de esta cámara usted estuvo con nosotros allí y fuimos precisamente a llevar esto de la mejor manera posible con una ley ya hecha y además es la segunda vez ustedes ya la habían llevado

anteriormente en otra legislatura por lo tanto pues no entendíamos que no se aprovechase esta oportunidad y se tirasen balones fuera proponiendo algo

que ya estaba hecho y la transacción final que nos proponen es verdad que deja fuera esa parte que nosotros tampoco hubiéramos tenido problema con volver a instar al gobierno de españa si además

se hubieran introducido medidas para plantear qué quiere hacer

general para con el amianto no hubiéramos tenido problema en apoyarlo pero no solamente esa cuestión eso se queda fuera pero la transacción que plantean

incluso por debajo de la iniciativa inicial del partido popular porque ustedes planteaban un plan ya digo que para nosotros insuficiente porque solo iba dirigido a las víctimas del amianto pero ahora ni tan siquiera es un plan es

a que haya más no sé cómo ha quedado la redacción a que haya mayor difusión sobre este problema bien nos parece bien pero esto es una cosa muy lógica y a que osalan yo no tengo muy claro si es osalan quien debería colaborar con esto

colabore con los ayuntamientos en la creación del mapa del amianto en nuestra iniciativa además se incluía la cuestión del mapa del amianto

pero no estoy seguro que la solución sea simplemente que osalan pueda ayudar

de los ayuntamientos a la hora de realizar este plan va mucho más allá de lo que les pueda ayudar osalan nosotros presentábamos una enmienda que como digo

tanto el que ha hecho este parlamento en una ponencia en la anterior legislatura como el que han hecho los agentes sociales tanto la asociación de víctimas como algunos sindicatos

que tenemos que abordar ya esta cuestión de manera integral nosotros lo planteábamos abordando yo creo que

decida abordar esta cuestión de manera integral una es las víctimas es verdad

en su intervención pero que no estaba en su iniciativa original y otra es la de los responsables de los que normalmente nunca se habla voy a empezar por esta última de los responsables porque es verdad que la mayor responsabilidad está en las instituciones

a pedir responsabilidades con esa proposición de ley al gobierno del estado pero no es menor verdad que las empresas también tienen su grado de responsabilidad

en los años setenta ya se sabía las consecuencias de este material las empresas lo sabían aunque fuera legal y las empresas lo utilizaron

y los trabajadores eran los que sí iban a trabajar sin saber durante muchos años lo nocivo que era este material para su salud pero las empresas sí lo sabían

era legal pero es que además las empresas tienen responsabilidad porque también incumplieron la legalidad en materia de prevención de riesgos laborales y en especial yo me voy a fijar en la obligación que tenían las empresas desde el año ochenta y cinco de registrar a los trabajadores

con el amianto ante la autoridad laboral esto se incumplió por la mayoría de las empresas muy pocas empresas registraron a los trabajadores que estaban expuestos al amianto y además las empresas que lo registraron no registraron a todos los trabajadores y trabajadores solo registraron a una parte de ellos lo cual dificultaba mucho y ha seguido dificultando la detección y el reconocimiento de estas enfermedades como profesionales

han colaborado a que no se reconozcan como enfermedades profesionales un montón de enfermedades cancerígenas que lo eran tenemos un grado de reconocimiento muy bajo solo por compararnos en alemania el catorce por ciento de las enfermedades cancerígenas son reconocidas como enfermedades profesionales en el conjunto del estado y en euskadi no llegamos al uno por ciento y esto no es casual esto es porque ha habido una política deliberada por parte de las empresas para que no se reconozcan como enfermedades profesionales el siguiente punto además de los responsables

el de las víctimas que aquí se ha mencionado nosotros pensamos que cuando se elabore esta política no nos podemos quedar solo en la compensación económica a las víctimas con los fondos de compensación etcétera el principal problema que tienen las víctimas es precisamente que no se les reconoce que sus enfermedades provienen del amianto tanto las profesionales como en algunos ejemplos que se han puesto de personas que no han

hay algunas cosas muy fragantes es decir el mesotelioma es una enfermedad que se produce exclusivamente por la inhalación del amianto y aun y todo los trabajadores tienen muchísimos problemas para que se les reconozca como enfermedad

los que tienen otro tipo de cánceres que también pueden ser producidos por otras cosas que no son amianto y ya pues ni qué decir las personas que no han adquirido estas enfermedades en puestos

porque se me acaba el tiempo es efectivamente el del amianto en sí

y no me voy a extender porque no tengo tiempo y porque algo se ha dicho el amianto sigue ahí y este parlamento es verdad hace quince años ya aprobó la cuestión de los mapas del amianto y los ayuntamientos no lo han hecho porque es muy dificultoso para ellos y por lo tanto nosotros en nuestra enmienda incluíamos esto porque pensamos que el gobierno vasco se tiene que mojar en esto y tiene que poner las medidas necesarias y decir que osalan les asesore

no es suficiente y yo no sé cómo osalan va a afrontar esto porque no es suficiente hace falta muchísimo más y hace falta un plan integral dos cuestiones más que nosotros incluíamos rápidamente la participación de los agentes sociales que no se incluya en las otras propuestas esto

es que en esta cuestión nos llevan mucha ventaja yo llevo

hablando de esta cuestión y ellos y la asociación de víctimas

se tiene que contar con ellos y el último punto que nosotros incluíamos

sino que estudiemos en ese plan la posible creación de un fondo autonómico porque nosotros no vamos a cantar victoria con el fondo estatal

que finalmente tendrá ese fondo estatal porque la ley sabemos cómo ha entrado

cómo va a salir y por lo tanto nos parecía interesante que nosotros hiciéramos también ese estudio yo ya para concluir decir que la propuesta que se ha transaccionado nos parece muy muy pobre es muy difícil que alguien se posicione en contra bien

liratekeela y décimos responsabilidades o quehaceres compartidos porque sabemos que en casa

y la culpa de que todavía sigamos conviviendo con el amianto no es de este gobierno ni de ningún otro gobierno vasco

es de quienes lo permitieron y además se enriquecieron a sabiendas de que estaban poniendo en riesgo la salud de los trabajadores y de las trabajadoras por eso

a quien le corresponde pero no nos olvidemos de que por desgracia aquí seguimos teniendo amianto seguimos teniendo suelos y edificios contaminados y lo peor es que seguimos teniendo personas enfermas por amianto tanto diagnosticadas como sin diagnosticar y esa parte creemos que sí nos toca son varias los ayuntamientos ya se han nombrado de araba bizkaia y gipuzkoa que se han puesto a trabajar en ordenanzas en planes en protocolos para el desamiantado

desagertuta dago ezer ezean geratu zen cuarenta y cinco mil euros que osalan destinaba a la fundación onkologikoa

en el ámbito de prevención de riesgos laborales en concreto para una investigación denominada nuevas herramientas aplicables al estudio de la población

por cierto proyecto reconocido y avalado por otros institutos y de aquello nunca más se supo

ni siquiera se ha comprometido a terminar los proyecto que ha iniciado todas estas cuestiones convendría retomarlas y planificarlas porque el amianto como hemos dicho convive con nosotros y nosotras ahora también es nuestro problema eh bildu ha presentado una enmienda a la totalidad donde se recogía en gran medida la propuesta de la señora lópez de ocariz

creemos que es necesaria la creación de ese nuevo instituto y no es una ocurrencia nuestra recuerdo que el dictamen de la ponencia también lo recoge

enmienda transaccional que se ha firmado pobre sí

floja muy floja diríamos muy floja campañas de información y prevención y asesoramiento de osalan

de la propuesta inicial y de las otras dos enmiendas a la totalidad que había se ha rebajado bastante porque se habla de campañas de información pero

la reparación que sea un primer paso bien de acuerdo será un primer paso pero como vayamos a este ritmo a estos pasitos tan cortos en el dos mil treinta no se qué habremos logrado aun así le recuerdo a la señora lópez de ocariz que cuando estén en disposición de llegar a un acuerdo con este grupo

a la totalidad que hemos presentado porque tendremos seguramente ocasión de llegar a acuerdos mejores que estos evidentemente no podemos votar en contra nadie puede votar en contra de este acuerdo pero

gracias presidenta en el pleno del nueve de febrero de este año volvimos aprobar la proposición de ley del fondo de compensación a las víctimas

única y como todos sabemos fue debido a un error cometido en el congreso de los diputados que rechazó la iniciativa en la mesa del congreso porque consideraban que podía afectar a los presupuestos generales de este año en españa por eso corregimos la redacción de la disposición final segunda de nuestra iniciativa

legislativa para que si había alguna duda todavía en su

no pudiera ser susceptible de interpretación de una mala interpretación y luego se acordó en la mesa del parlamento que a petición de las asociaciones de víctimas de afectados por el amianto en euskadi

iniciativa directamente por una representación de los diferentes grupos parlamentarios de la cámara para que se visibilizara mucho más esta iniciativa realizada en este parlamento iniciativa importante y que además se presentó

el quince de marzo pasado y luego pudimos tener una reunión conjunta con representantes de todos los grupos parlamentarios de todos los grupos en el congreso de los

explicarles más claramente a todos que efectivamente esta iniciativa legislativa no tenía ninguna repercusión en los presupuestos generales del estado de este año en ningún caso a ver si así se puede admitir su entrada en el congreso de los diputados y puede ver esta iniciativa muy importante para las víctimas del amianto dentro del informe de finalización de la ponencia sobre la creación del fondo de compensación para

se recogía dentro de sus conclusiones después de su debate

legislatura que era necesario que ese fondo de compensación debía tener nacional además de recoger veintiuno recomendaciones en sus conclusiones y en la recomendación sexta del dictamen de la ponencia se propone que ese fondo de compensación tiene que ser estatal y no de comunidad autónoma

para defender ese carácter estatal era que el uso del producto fue autorizado por el estado y reconocido como enfermedad profesional por la seguridad social por lo que alguna responsabilidad debería de asumir el sistema de las consecuencias derivadas de esa situación y además se recalcaba la dificultad de circunscribirlo a una

como segunda razón se argumentaba que si no tiene ámbito estatal se pueden generar desigualdades en las diferentes comunidades autónomas y se daba una tercera razón y se decía que además existen empresas unas de ámbito estatal y otras no por lo que lo más conveniente sería

estatal con fondos provenientes de la seguridad social y de las mutuas habrá que definir su financiación pero eso ya no le corresponde al trabajo de esta cámara sino que tendrá que ser el congreso de los diputados el que defina cómo se puede nutrir este fondo de compensación

que estamos ante un sistema de seguridad social de reparto es decir cotizamos todos para que todos recibamos prestaciones

o no contributivas y es difícil trocearlo por comunidad autónoma por eso es lógico que ese fondo de compensación sea estatal y cubierto por la ley de seguridad social

aunque el fondo pueda resarcirse más tarde judicialmente aunque ello cueste tiempo y con aquellas empresas que han ocasionado el daño

un ámbito nacional yo no entiendo que en la iniciativa planteada señor hernández por elkarrekin podemos hagan referencia a la propuesta de crear un fondo de compensación a nivel de comunidad autónoma no ha venido con el resto

a madrid su grupo a solicitar la creación de ese fondo de compensación a nivel nacional el quince de marzo

no es congruente hay que ser usted hablaba de seriedad en su exposición y yo le digo hay que ser serios y coherentes con lo que décimos

ir a presentar la defensa del fondo de compensación a nivel nacional y luego en su enmienda a la totalidad decir y proponer que se cree un fondo de compensación a nivel de comunidad autónoma luego le preocupa

para el mapa del amianto y yo creo que el establecimiento de unas fechas en el calendario no son tan necesarias porque le corresponde a cada ayuntamiento decidir en qué momento le viene bien

y ellos decidirán libremente cuándo pueden hacerlo o no que sería conveniente que poco a poco lo vayan haciendo pues sí pero

una serie de medidas para ayudarles a realizarlo pero realizarlo cuando ellos consideren que pueden

que debatimos se presentó ya como hemos dicho en el pleno del año pasado del diez de febrero

socialista donde se instaba al gobierno de españa a la creación de ese fondo de compensación nacional en esta iniciativa el grupo eh bildu presentó una enmienda a la totalidad idéntica a la que hoy ha presentado

del instituto vasco del amianto nuestro grupo parlamentario no está de acuerdo con esta iniciativa porque en la recomendación once del dictamen de la ponencia

a que una vez creado ese fondo de compensación se podrá valorar la creación de un instituto nacional en primer término del amianto de carácter tripartito

estudios epidemiológicos y por último la gestión del fondo

es decir que si todavía no se ha creado el fondo a nivel nacional

evidentemente es necesario ese instituto nacional del amianto porque no hay indemnizaciones todavía que gestionar a nivel del estado entonces

vasco del amianto cuando ni siquiera tenemos ese fondo de compensación a nivel nacional cuando esas indemnizaciones serán aprobadas a nivel nacional y lo lógico

un instituto nacional del amianto pero en su momento sin embargo la vigilancia de la salud y el control del amianto en nuestra comunidad autónoma se sigue realizando porque

osalan y la inspección de trabajo y si hablamos del recargo de prestaciones no le va a corresponder tampoco a este instituto

a corresponder al instituto nacional de la seguridad social a propuesta de la inspección de trabajo no tiene por tanto ningún sentido la creación ahora mismo de este instituto

nosotros hemos apoyado esta enmienda transaccional

en la que se recogen una serie de medidas y unos pasos a dar dentro de nuestra comunidad autónoma con independencia del trabajo que tienen que realizar y que ya les hemos remitido

y ahí se le insta a intensificar al gobierno vasco las campañas de información y prevención sobre la exposición de los trabajadores al amianto y ese trabajo se realizará a través de

del trabajo que realiza la inspección de trabajo que también hace funciones de asesoramiento y no únicamente de sanción y también a que desde osalan asesoren a los ayuntamientos que lo soliciten en la elaboración de mapas amianto en sus municipios yo creo que esto es importante y es que además ya lo están haciendo el municipio que ha querido acercarse a osalan para asesorarse

se harán de una forma directa e individualizada y ahora a través de esta enmienda será conocido por todos

la tenían abierta y la van a seguir teniendo abierta después de la aprobación de esta enmienda pero nosotros creíamos que

la elaboración de ese mapa pero solo centrada en un calendario a nosotros nos preocupa la ayuda directa a esos ayuntamientos

llevar a cabo la realización de ese mapa pueden tener el asesoramiento directo de osalan y la tutela

realizada por osalan con toda su experiencia para ayudarles a poder realizar todo ese mapa de amianto que no es nada sencillo que es algo bastante complejo y luego completarla

en nuestra comunidad autónoma y que yo creo que van recogidos y plasmados dentro de la iniciativa y de la enmienda transaccional

y se va aprobar hoy con el apoyo del partido nacionalista
vasco del partido socialista y del grupo popular nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea eusko abertzaleak aiartza jauna zurea da hitza

bere toxizitatea el riesgo de su toxicidad

sus fibras pueden ser inhaladas y depositarse dentro del organismo el organismo es incapaz de eliminar esa fibra y se da una evolución durante el periodo de latencia hacia la enfermedad se dan diferentes tipos de lesiones algunas mortales

en la vida laboral de la persona afectada también pueden producir lesiones

desde que en la unión europea se prohíbe oficialmente el uso del amianto en dos mil cinco la única actividad permitida

retirada realizada por empresas específicamente autorizadas y registradas

puede seguir dañando la salud al existir aún gran cantidad de material que lo contiene el número de afectados es realmente elevado y la estimación nos dice que seguirán aumentando

a producto extremadamente tóxico con miles de personas enfermas o en estado de latencia

de los afectados de las afectadas sus familias las personas en estado latente toda la sociedad en definitiva

en resumen creo que nos podríamos hacer fundamentalmente dos preguntas qué se puede hacer en el ámbito del amianto y qué se está haciendo realmente

los ámbitos de actuación se puede hacer prevención de la exposición se puede hacer vigilancia de la salud y se puede hacer compensación a los afectados y afectadas la segunda pregunta qué se está haciendo cuáles son en definitiva las acciones realizadas en estos ámbitos en la prevención de la exposición a grandes rasgos se están

se utilizan procedimientos de retirada por empresas autorizadas registradas y se trasladan a depósitos controlados

de vigilancia de la salud de los trabajadores y trabajadoras expuestos con la información de su historia clínica como ciudadanos lo que conlleva un conocimiento más sistemático de los posibles daños

ocupacional se están realizando exámenes de salud específicos para vigilar la posible aparición de patología relacionada con la exposición

expuestas al amianto en lo referido a la compensación el caso del amianto es particularmente complejo en primer lugar el tiempo de latencia entre la exposición y la aparición de la enfermedad es extraordinariamente largo

que se producen en personas que no han estado expuestas profesionalmente al amianto siendo la causa de la exposición la contaminación ambiental que en muchos casos no tienen un culpable definido en otros sí y

es por ello que en el caso de los afectados por amianto los procedimientos de valoración e indemnización de los sistemas de compensación

se ven obligadas a recurrir a los tribunales para lograr el resarcimiento solo les queda litigar por daños y perjuicios contra la empresa en algunos casos no

en otros muchos afectados no consiguen sobrevivir a largo proceso judicial

que han tenido los mismos niveles de utilización de amianto y el mismo impacto nocivo para las personas han constituido fondos de compensación específicos con el objetivo de compensar a las víctimas la ponencia en este parlamento como ya se ha dicho se constituyó al objeto de estudiar la posible creación

su conclusión principal es clara necesidad de creación en el estado de este fondo de compensación sobre esta cuestión hay un cambio sustancial en los últimos días por ello también señor hernández el cambio de nuestro texto nosotros habíamos presentado un texto

y hoy apoyamos un acuerdo es sustancialmente diferente por qué porque en aquel momento estábamos en otra situación en qué situación estábamos estábamos

por la inconcebible decisión de la mesa del congreso de no admitir a trámite la proposición de ley que se le envió desde este parlamento esto nos obligó a renovar el compromiso en esta cámara cuestión que hicimos con posterioridad el quince de marzo un día muy importante relacionado con el amianto el quince de marzo fuimos a

esa iniciativa legislativa en el congreso en primer lugar yo destacaría la imagen de unidad digámoslo así materializada en esa furgoneta en la que íbamos no solamente registramos esa iniciativa

una posterior reunión en la cual estuvieron los representantes de las asociaciones de víctimas los portavoces de los grupos parlamentarios en el congreso y nuestra delegación la delegación del parlamento vasco el resultado

tres resultados primero el reconocimiento a las víctimas en el propio congreso en segundo lugar el reconocimiento en el congreso y por los representantes del congreso al trabajo

y en tercer lugar un compromiso explícito de los portavoces en el congreso fundamentalmente el que más nos interesaba es el compromiso que tenían miembros en la mesa pero un compromiso unánime así lo entendí yo al menos de dar impulso trámite a la iniciativa

ese mismo día casualidades de la vida

en el pleno de control que transcurría en el congreso de los diputados hubo una pregunta del portavoz de nuestro grupo parlamentario en el congreso aitor esteban al presidente del gobierno sobre esta cuestión

dispuesto a tratar este asunto a tratarlo en serio recojo parte de su respuesta

todo esto en el ámbito de la compensación el valor del acuerdo de hoy a mi juicio mejora en lo concreto los ámbitos

y de vigilancia esto es señor hernández un planteamiento integral prevención

y compensación a mí me parece bien el esquema

fundamentalmente es el mismo esquema a mí juicio un buen acuerdo a mí juicio no es una oportunidad perdida a mí juicio

su exigencia sí porque mire nosotros hace un año proponíamos en esta cámara la elaboración de un plan de medidas para afectados del amianto

trabajo vivienda medio ambiente salud hablamos de los afectados las personas y de todos los componentes que rodean

y las consecuencias que su uso ha tenido desde distintos ámbitos la respuesta fue no no había otro objetivo que

no había ojos para otra cosa en esta cámara era así la realidad y nosotros

para los afectados porque se nos ocurrió es que a los afectados en el gobierno anterior

se ofreció por parte de la consejería a los afectados la elaboración de un plan eso está escrito eso nos lo han dicho los afectados en la propia comisión no nos hemos inventado nada hemos elegido una figura que ya la habían ofrecido a los afectados por lo tanto

ofrecido a los afectados podía tener mejor aceptación no nos estábamos inventando nada esa fue la realidad

seguimos con el mismo interés porque aquí hay muchas cosas que podemos hacer y si queremos decir euskadi libre de amianto tenemos un trabajo impresionante por delante

porque seguir insistiendo en el plan tal y como entendemos un conjunto de medidas global era no y nosotros queremos avanzar

hacemos dos medidas y más adelante presentaremos otras porque vamos a insistir

y hoy tenemos dos medidas una me decía intensificar las campañas de información y prevención sobre la exposición de los trabajadores al amianto

pero es que los técnicos en este caso nos dicen que

y que por eso hay que insistir en la formación que es fundamental por lo tanto también es verdad que las empresas están obligadas a hacer esta formación ir insistiendo en la formación de sus trabajadores pero sí que es verdad que a veces hay una cierta relajación

no lo conocía yo pero una persona técnica me insistió mucho en esa necesidad porque es una manera de prevenir y hay que trabajar también en la prevención además de sacar al amianto de todos los espacios donde está latente por lo tanto

esa es la realidad en lo que nos hemos afrontado en cuanto a

no compartimos la idea de generar más estructura administrativa creemos que hay que buscar herramientas donde podamos hacer

que llegado un tiempo y una vez de vista la experiencia

puede cumplir ese fundamento ese conjunto de funciones y puede asesorar es

tener que hacer aquí nuestros protocolos nuestros sistemas de información de formación de cómo informar a los habitantes que están alrededor de ese espacio donde

yo creo que ahí sí tiene que haber un arrope un arrope importante los técnicos municipales en algunos casos tendrán alguna formación los equipos de prevención de la salud de los ayuntamientos tienen el volumen que tienen la capacidad que tienen yo creo que es muy bueno que primero

se generalice el hecho de que es obligatorio hacer los mapas del amianto en los ayuntamientos

la salud de todos los ciudadanos de los que estamos y de los que nos visitan

para tener contaminación hoy los informes nos dicen que muy poca exposición también puede ser peligrosa por lo tanto estamos ante un problema muy muy serio y mire ya es que casi dejo de darle importancia a que sea un plan dos medidas hoy dos medidas hoy dentro de unos meses vemos la necesidad de hacer una evaluación de determinados parámetros pues lo presentaremos no pasa nada lo iremos haciendo en trozos pero creo que es un avance porque venimos de un no que no tenía alternativa y creemos que en un año pasar a dos medidas que se puedan avanzar pues nos parece por lo menos eso
avanzar y es a lo que estamos eskerrik asko lópez de ocariz anderea elkarrekin podemos

por empezar por algún sitio me gustaría aclarar

y yo creo que esto no es en absoluto incoherente con plantear el estudio de la posibilidad de un fondo autonómico y creo que lo he explicado antes e intentaré explicarlo en primer lugar porque no sabemos cómo va a acabar la iniciativa en el congreso creo que lo he dicho antes y en segundo lugar porque yo realmente no creo que sea incompatible y cuando alguno de los agentes sociales que más han trabajado este tema nos planteaban esta posibilidad en la que llevan también insistiendo muchos años

de recibo incluirlo porque no sabemos la cobertura que va a dar el fondo estatal cuando sea creado en cualquier caso también

al congreso a llevar el plan ustedes señor aiartza ha dicho que presentaron aquí una enmienda que hoy

al negociar con el partido popular porque todavía no se había ido al congreso nosotros en nuestra iniciativa

con el tema del mapa amianto no hacemos como usted dice simplemente poner unas fechas o calendarizar o ponerles unas fechas a lo obligatorio a los ayuntamientos al contrario lo que

está escrita es instar al gobierno vasco a que colabore en la ejecución de esos planes de esos mapas del amianto

en eso se puede efectivamente poner fechas porque estamos hablando de una ley que aprobó este parlamento hace quince años por lo tanto que quince años sin que se haga creo que han dado el dato de que dos ayuntamientos que yo creo que el de san sebastián no lo ha hecho porque

allí en el ayuntamiento han insistido la última vez ha sido este mes de marzo que han vuelto a presentar una iniciativa para que se haga por lo tanto quince años pues yo creo que ya es tiempo suficiente como para que sí podamos decir oye hay que poner unas fechas

y por eso nuestra enmienda y no lo hacía ni lo hace finalmente la enmienda que ustedes hacen porque yo insisto me parece bien me parece un avance

la solución no es que osalan simplemente pueda asesorarles porque creo sus necesidades son muchos mayores nosotros pensamos que no es suficiente

nosotros pensamos que eso es necesario coincidimos por supuesto usted ha dicho prevención vigilancia y compensación yo en mi intervención anterior he insistido mucho en el reconocimiento del origen de la enfermedad

pero eso no es prevención y vigilancia es detección y reconocimiento porque yo he insistido mucho en que hay una política deliberada por parte de las empresas y

en el reconocimiento y por eso yo daba unos datos concretos de que aquí las enfermedades profesionales solo hay un uno por ciento en las enfermedades de cáncer reconocidas como profesionales mientras que en otros lugares de nuestro entorno

por esto por eso yo creo que hace falta algo más y por eso yo creo que su iniciativa se queda corta y por eso yo decía que nos parecía una oportunidad perdida

que ustedes podían haber ido mucho más allá estoy absolutamente convencido y por eso no comparto con usted sí comparto con usted de que la propuesta sea

es un pasito muy pequeño y con un problema muy grande a este ritmo de pasitos llegaremos muy tarde en cualquier caso nuestro grupo como ya he dicho

en incluir el tema del instituto nos parece bien no vamos a votar en contra de la transacción porque efectivamente como se ha dicho aquí es muy complicado

pero que nos parece muy insuficiente lo que sí vamos a pedir y a aprovechar

este tema muy en serio y que el gobierno no recurra las sentencias cuando se reconocen

también casualmente lo del congreso con sus compañeros la pregunta creo que no fue casual me imagino que la tenían preparada me parece muy bien pero casualmente antes de ayer yo leí en un periódico que la viuda de un chapista que trabajaba en los talleres de la ertzaintza y que había sido reconocida

el gobierno la ha recurrido hombre pues yo creo que

tampoco hace falta esto simplemente eso mi grupo no votará en contra pero creemos

bueno señor hernández he comentado y usted conoce que el dictamen de la ponencia ya estudió durante dos legislaturas

había razones o argumentaciones para crear ese fondo a nivel nacional o a nivel de comunidad autónoma se debatió muchísimo durante unos cuantos años y el resultado de todo ese debate se recogió en el dictamen

que le invito a leerse en profundidad porque está muy bien explicado todo esas argumentaciones entonces

evidentemente hablar ahora en una propuesta de un fondo de compensación a nivel de comunidad autónoma no tiene ningún sentido porque dentro del propio dictamen de la ponencia se recogía por una serie de razones que además

las he expuesto en mi primera intervención porqué tenía que tener un ámbito nacional y no un ámbito de comunidad autónoma con lo cual ahora mismo no tienen ningún sentido hablar de ese fondo a nivel de comunidad autónoma y nosotros no hemos retirado

sino que evidentemente como hemos ido en ese intermedio a madrid a presentar en el congreso de los diputados como usted ha señalado

aquí y hemos trabajado para meter y dar pasitos adelante y meter

ya hemos puesto todos de manifiesto para avanzar y en el caso del mapa del amianto es bueno que todos los ayuntamientos cuando decidan el realizar y entrar a la realización del mismo

asesoramiento por parte de osalan que además tiene mucha mucha experiencia en asesoramientos

en materias de exposiciones a amianto con lo cual ahí van a estar perfectamente apoyados en todas las dudas que ellos tengan

para poder ayudarlos no se necesita para eso ningún plan ahora mismo para realizarlo es que además ya lo he dicho es que al que lo ha pedido ya les están asesorando

va a conseguir con esto es que se conozca por los distintos ayuntamientos que tienen esa herramienta tienen esa posibilidad y además osalan está dispuesto a hacerlo como lo está haciendo

por lo tanto en ese sentido pues tampoco se da un avance con lo que recoge la enmienda transaccional eso sí que es un avance no el hacer un calendario es que un calendario de qué sirve si cada ayuntamiento tiene su ritmo por cuestiones económicas

para que les asesore que llevan trabajando tanto osalan como la inspección de trabajo mucho tiempo en esa materia señora

madrid evidentemente después de la presentación de nuevo de la iniciativa

consiga también el apoyo para entrar dentro del congreso de los diputados y se pueda conseguir que se

cree ese fondo de compensación a nivel nacional y luego

de trabajo y justicia ya puso de manifiesto en la comisión

un control por parte del departamento de las enfermedades profesionales y entre ellas también las derivadas del amianto yo he manifestado señora blanco que evidentemente en la enmienda

nacional del amianto yo entiendo que a ustedes siempre les dé un poco sarpullido hablar de institutos a nivel nacional y prefieran

se van a reconocer y hemos pedido un fondo a nivel nacional y se van a reconocer a nivel nacional

ese instituto tiene que tener un ámbito nacional es obvio y es clarísimo en ese sentido y para qué se va a crear aquí para qué para nada para gastarse un dinero para que no tenga esas competencias y lo que se pueda hacer aquí

con crear ese instituto vasco no se avanza tenemos un osalan que puede hacer perfectamente todas las medidas que hemos dicho hoy aquí y que puede

en ese sentido cuando se cree el fondo de compensación y vayamos avanzando ya iremos viendo pero ahora para qué es que no tiene ningún sentido por eso sí que avanzamos con la enmienda transaccional que nosotros vamos a apoyar hoy y por eso creo que es positiva y que

la protección y vigilancia y control en la exposición al riesgo

eserlekutik dos cuestiones muy brevemente dos cuestiones una técnica referida a algo que ya

no retiramos una enmienda sino que hacemos transformar

y otra una cuestión esencialmente semántica o si quiere de esquema usted habla de un esquema víctimas

amianto existente en segundo lugar y responsabilidades públicas y privadas realmente nosotros no tenemos ningún problema con ese esquema pero el esquema que nosotros planteamos es un esquema

un esquema de vigilancia a la salud y un esquema de compensación a modo de ejemplo compensación exige determinar responsabilidades tanto públicas como privadas con lo cual cuando usted se refiere al esquema

un esquema de menor alcance entiendo que no tiene por qué ser así dependerá de la profundidad de esa prevención de la profundidad

vigilancia a la salud y de la profundidad o la calidad de la compensación no tengo la más mínima duda en cualquier caso